es innegable la importancia de la mujer en el desarrollo rural de euskadi la existencia de las mujeres en diferentes actividades en un entorno rural es síntoma de desarrollo y si trabajamos por garantizar la presencia de la mujer en el sector agrario estaremos por ende apoyando y afianzando el futuro de un medio rural en euskadi sin embargo tenemos mucho por corregir la proporción de mujeres titulares de explotaciones

ya que en muchas ocasiones se trata de trabajos no visibilizados como son labores de transformación pero sobre todo tareas de comercialización

por tanto debemos además promover el acceso de las mujeres agricultoras a la titularidad de explotaciones siendo esta una de las prioridades que se recogen en la ley otro de los ámbitos de intervención es el de las personas contratadas en las explotaciones agrícolas ya que la contratación de mujeres en este sector es significativamente

en cuanto a la situación de jóvenes baserritarras siguen produciéndose

ya que en las explotaciones en manos de jóvenes el porcentaje de mujeres titulares es realmente inferior

debemos tomar medidas para que las mujeres jóvenes cuenten con oportunidades laborales que les permitan si así lo desean permanecer en entornos rurales

además la participación de las mujeres en los órganos de decisión

y su participación en estos órganos de decisión además se plantea la necesidad de contemplar factores diferenciales

se trata de garantizar la salud de las mujeres en ese trabajo agrario este estatuto de las mujeres agricultoras no tiene precedentes normativos pese a que abundan recomendaciones en todos los sentidos e incluso mandatos para que se elaboren así

apartado cuatro del tratado de funcionamiento de la unión europea se señala que los estados miembros pueden mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades autónomas o a evitar o compensar desventajas en la carrera profesional por razón de sexo el reglamento de la unión europea

relativo a la ayuda de desarrollo rural a través del fondo europeo agrícola de desarrollo rural el conocido como feader recoge además

subprogramas temáticos que aborden la necesidad específica de las mujeres en las zonas rurales hay que señalar además que dentro de nuestro ámbito normativo la ley cuatro barra dos mil cinco de dieciocho de febrero para la igualdad de

y regula una serie de medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades

a promover la autonomía y fortalecer la posición social económica y política de aquellas

entendida como la prohibición de discriminación la igualdad de oportunidades el respeto a la diversidad y la diferencia

la acción positiva la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo

en los distintos ámbitos de toma de decisiones y además por su parte la ley diecisiete barra dos mil ocho de veintitrés de diciembre de política agraria y alimentaria consagra el apoyo firme y decidido a las mujeres agricultoras

y promocionar con carácter preferente teniendo por tanto en cuenta todas estas leyes y normativas el estatuto que hoy se presenta tiene treinta y uno artículos

una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales se estructura en seis títulos dedicados a disposiciones generales titularidad de las explotaciones agrarias representación de las mujeres en el sector derechos sociales reconocimiento y visualización de su trabajo dedicado a la comisión de seguimiento del mencionado estatuto en el título primero de disposiciones generales se define el objeto del estatuto y los principios que le inspiran

y otras que recogen conceptos que aunque ya definidos en otras normas se repiten aquí para facilitar la comprensión del texto

trata del acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias recoge para dar coherencia al texto los requisitos establecidos en la ley diecinueve barra mil novecientos noventa y cinco del cuatro de julio de modernización de las explotaciones agrarias

así como las medidas de fomento del acceso de las mujeres agricultoras a la titularidad la figura de titularidad compartida está llamada a ser un instrumento de gran importancia en la consecución de una igualdad de derechos efectiva

trabajan para la explotación se acojan a este régimen de titularidad mediante la priorización de estas explotaciones en la concesión de ayudas y asignaciones

se distinguen aquí tres áreas de intervención que reciben un trato diferenciado en primer lugar la administración y sus empresas

y en tercer lugar las empresas privadas las tres tienen un denominador común y es el de hacer efectivo el derecho de las mujeres a participar en la política agraria

válidas en el impulso de políticas que representen sus intereses y necesidades la diferencia en el tratamiento en las diferentes áreas en las tres áreas mencionadas viene dada tanto por los objetivos que se consideran alcanzables en diferentes plazos como sobre todo por las medidas mediante las que se pretende conseguir tales objetivos

de evaluar el cumplimiento en el título cuarto referido a derechos sociales se incide en una serie de áreas de trabajo que se considera conveniente tengan un tratamiento específico en el sector agrario

así en materia de conciliación corresponsable se garantizan programas que aseguren la actividad agraria o ante problemas de violencia contra las mujeres o acoso

en un ámbito mucho más cerrado y silenciado y hace que sea realmente difícil su prevención y atención por tanto se realiza un capítulo específico para ello

que han realizado y que realizan las mujeres en el sector agrario

lo previsto en la ley cuatro barra dos mil cinco para intentar asegurar que se tenga siempre en cuenta la realidad del trabajo de las mujeres en un sector en el que han sido especialmente

y por último el título sexto crea una comisión de seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y se asignan a la comisión tareas concretas de evaluación

hemos votado a favor de este proyecto de ley del estatuto de la mujer agricultora porque recoge los derechos de las mujeres agricultoras su reconocimiento profesional

profesionales sociales y fiscales nos parece oportuno este proyecto de ley porque concreta las obligaciones de las administraciones para garantizar

agraria este proyecto de ley obedece al mandato y recomendaciones de varias directivas europeas que se refieren a la aplicación del principio de igualdad

y mujeres en el ejercicio de una actividad autónoma en materia de seguridad social de empleo y de contratación la ley diecisiete barra dos mil ocho de veintitrés de diciembre consagra el apoyo decidido a las mujeres agricultoras

a esta cámara al gobierno elaborar el estatuto de la mujer agricultora y sus objetivos

recoge entre sus principios la igualdad de trato la igualdad de oportunidades integración de la perspectiva de género el respeto a la diversidad y la diferencia la acción positiva la eliminación de roles y estereotipos

y la representación equilibrada en los distintos ámbitos de toma de decisiones

y que va dirigida a todas las actividades y profesiones en las que la mujer decida participar

de la ley estatal de la ley treinta y cinco barra dos mil once sobre titularidad compartida

se adapta a la normativa autonómica estatal y europea desde el grupo popular también compartimos los objetivos de este proyecto de ley

promover el acceso a la titularidad de la mujer agricultora favorecer la contratación de mujeres

en los órganos de decisión de las organizaciones sindicales organizaciones agrarias cooperativas empresas

esta ley como se ha dicho cuenta con treinta y uno artículos nosotros hicimos enmiendas algunas fueron aceptadas y otras no había un grupo de enmiendas que

porque un tercio del articulado de esta ley es un corta y pega de la ley dos mil cinco de igualdad

enmiendas porque aclaran el texto francamente

deba ser o deba contener un porcentaje de artículos que sean corta y pega de leyes básicas transversales la exigencia relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa debe procurar

sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas este proyecto de ley

técnicamente un producto legal un producto legal nuevo debe contener normativa nueva los anteproyectos de ley ya son informados previamente

por lo tanto creo que hay base suficiente para que el proyecto que llegue aquí

explicado previamente en cuanto a este asunto por eso seguimos sin entender y creemos que no no tiene lugar

un tercio de artículos que son corta y pega de otras leyes nuestras enmiendas estaban encaminadas a lograr una ley aseada limpia de elementos

nueva normativa no obstante aunque esto no ha sido admitido nosotros entendemos que el objetivo de la ley se cumple y que es bueno tener un estatuto una ley del estatuto de las mujeres agricultoras en esta comunidad autónoma

gracias presidenta egun on señorías buenos días a todas y a todos

este quince de octubre es el día internacional de las mujeres rurales y este quince de octubre damos relevancia legal a este papel imprescindible y hasta ahora poco reconocido de la mujer en el mundo de la agricultura hoy pues por motivo doble nuestro reconocimiento

cuya contribución es decisiva para que el desarrollo del sector esté y sea perfectamente diseñado estamos convencidos de que este paso que damos es asimilable a otros dados

en favor de la igualdad de la mujer agentes claves para conseguir los cambios económicos ambientales y sociales necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible esta es una ley en este camino

no solo es fundamental para el bienestar de las personas familias y comunidades rurales sino también para la productividad económica en general porque en este futuro en el que tenemos que pensar las mujeres juegan

papel fundamental en el diseño del nuevo modelo social rural y el nuevo modelo de agricultura familiar multifuncional y sostenible que plantea la nueva política agraria común la aprobación de la ley del estatuto de las mujeres agricultoras responde a la necesidad de afrontar la discriminación que sufren las mujeres en el sector agrario

profesional y su estimación social así como el ejercicio efectivo de sus derechos profesionales sociales

como ya se ha dicho la presente ley tiene como principios la igualdad de trato la igualdad de oportunidades y la integración de la perspectiva de género y como ya he apuntado reconoce legalmente lo que ya se venía dando aunque sin derechos

lo que puede aportar la ley para el futuro para que las mujeres jóvenes

la producción agrícola sin el temor de la discriminación que han podido conocer en los caseríos en tiempos pasados

realizamos en numerosas ocasiones declaraciones en favor de la producción ecológica de la artesanal del comercio de proximidad pero para que todo esto sea posible es necesario que dotemos de instrumentos suficientes

lo hace es una apuesta clara por el relevo generacional el grupo socialista cree esta ley y además de haber partido

hemos aportado lo que consideramos de interés para mejorar el texto

el actual ejecutivo lo que hemos aportado son enmiendas referidas a la promoción del acceso a la titularidad de la explotación agraria

la modificación del modelo tradicional del reparto de tareas implantar las medidas necesarias para garantizar la salud de las mujeres en el trabajo

o sanciones de su vulneración la formación en el ámbito agrario la participación de las mujeres en los órganos de decisión

ya saben ustedes que realmente genera grandes desigualdades entre mujeres

fomentar la afiliación de las mujeres en la seguridad social el reconocimiento o

en el ámbito agrario desde nuestro grupo socialistas vascos nos parece importante imprescindible

fomenten el acceso de las mujeres a la titularidad registral de las explotaciones así como la titularidad de las ayudas pagos derechos de producción primas cuotas u otros medidas de efectos equivalentes que correspondan a sus explotaciones el espíritu originario de esta ley ya se trajo en el dos mil diez se trabajó y de desarrolló con el gobierno del pse

se trabajó durante mucho tiempo se contó con las diputaciones forales

emakunde asociaciones de mujeres del sector rural entre otros dada la importancia que tiene para su mayor y mejor desarrollo la igualdad

ha recogido lo esencial de esta propuesta y finalmente ha acabado aceptando las sugerencias de otros grupos esencialmente el socialista con lo que el estatuto final es el que ya estaba esbozado

así que si algún pero tuviéramos que poner es tan solo el retraso podía haber sido antes pero bienvenido el espíritu de acuerdo y el resultado final

en el sector agrario y sobre todo en el papel de los derechos de la mujer agricultora derechos que tiene bien merecidos

de este mismo año efectuado por la diputación foral de bizkaia

se aborda con decisión toda una problemática que termina definiéndose como enormemente específica y que en su grave particularidad llega a percibirse como normal en el propio entorno en que se produce estamos hablando por tanto de una especificación de una especialidad en el entorno de la desigualdad de las mujeres desigualdad que sabemos de momento

pero es que en el mundo agrario y en el mundo rural es por decirlo de alguna manera superior en grado y con factores específicos como la proximidad y el conocimiento social

proximidad y lejanía dos ideas contradictorias pero al tiempo dos divergencias para un mismo daño se produce por tanto una especificidad en la problemática de la mujer agricultora y del mundo rural que exigía una específica legislación

aprobada en el dos mil cinco en este parlamento de hecho ha parecido necesario reiterarlos para reforzar la ley que hemos aprobado lo reiterativo si es para justicia y por la igualdad nunca está de más emakumeak nekazal sektoreari eskainitako

dituztenean si no desde siempre desde hace mucho tiempo

la mujer se ha responsabilizado de las tareas del campo tanto en la producción en la transformación como en la comercialización no estando en la mayoría de los casos seguridad social lo que le privaba no solo de la posibilidad de una jubilación sino de ser titular o cotitular de la empresa que gestionaba o cogestionaba apareciendo en la mayoría de los casos el hombre como único responsable de la misma

secundario que para nada ha sido ni es cierto lege proiektu hau adostasun zabalak bidali zuen jaurlaritzak

emakume nekazariekin reitero mi agradecimiento a todas y todos los que han colaborado en la redacción del texto definitivo

claro y nítido a los hombres pues de nosotros se espera un superior esfuerzo para la igualdad

a las que se dota de una herramienta fundamental para reclamar y avanzar hacia la tan ansiada y necesaria igualdad sin entrar en ningún debate

en los trámites anteriores de ponencia sin entrar en cuándo se pudo hacer quién aportó más y otras cosas que se han podido decir

lo hemos hecho y la unanimidad es un valor que hoy resulta fundamental en este país en esta sociedad quiero terminar con una

presidenta de la asociación de emprendedores rurales que dijo pienso que no debería existir ninguna ley ni un día de la mujer ni rural

cuando no existan ese día habremos llegado a la igualdad en todos los aspectos y a pesar

egiten du porque eso fue lo que pasó hace dos semanas cuando interpelamos al consejero

un estado del bienestar sin recortes ni una sola propuesta ni atisbo de la posición de este gobierno sobre cómo sostener y desarrollar un verdadero

el consejero se limitó a repetir datos macroeconómicos a exponer las limitaciones legales y a hacer alarde de aquello que él considera reflejo de crecimiento y mejora en definitiva como se dice futbolísticamente patadón pa lante y que siga el partido y nos preocupa

que un gobierno al que se le interpela sobre las políticas tributarias que deben ser sostenimiento de las políticas básicas para el desarrollo de una sociedad igualitaria

una carencia total de interés sobre el tema y dé una respuesta

porque uno se compara con el estado español que apenas supera los mil ignorando

los dos mil cien de bélgica los más de tres mil setecientos de dinamarca

de finlandia y mejor ni hablamos de los cuatro mil setecientos de noruega y otro tanto pasa con la sanidad

quedan muy lejos de los dos mil ochocientos de francia los cuatro mil de dinamarca y no digamos

dio zuzen erantzuten porque el sistema que el pnv

para contrarrestar el camino iniciado en gipuzkoa por eh bildu por un sistema más justo y con la vista puesta en el bienestar real de la sociedad

no da más este sistema no solo no cumple con su función redistributiva sino que ni siquiera cumple con los objetivos de recaudación que ustedes mismos pusieron solo gipuzkoa prevé cumplir con sus objetivos de recaudación

el territorio que de la mano de euskal herria bildu y con el apoyo del partido socialista apostó por unos impuestos más progresivos equitativos y redistributivos cierto es que el partido socialista después reculó y de la mano del partido nacionalista y partido popular instauró el actual sistema fracasado pero no nos cabe la menor duda de que la buena gestión realizada por el anterior gobierno foral es la base de la mejor marcha actual

no se puede mirar a otro lado y alegar que no hay más dinero lamentarse constantemente de las estrecheces presupuestarias y de que la situación nos obliga a hacer ajustes cuando las personas y familias en situación de pobreza y ausencia de bienestar han aumentado un cuarenta y uno coma uno por ciento en los últimos cuatro años y son ya

la tasa de pobreza real en nuestra comunidad ha pasado del cuatro coma ocho al cinco coma nueve cuando hay más de ciento veintisiete mil cuatrocientos personas

un cuarenta y dos por ciento más que en el dos mil ocho no se puede decir que una vez más tocan ajustes y que ya vendrán tiempos mejores y lo que es peor todavía lo que no se puede es engañar a toda esta gente diciendo que no hay recortes en las políticas sociales

y ellas los que sufren estos recortes a diario egoera honetan jakina badagoela zer egin zerga sistema aldatzea

lo dije en mi interpelación bizkaia gipuzkoa y araba pueden decidir noventa y cinco por ciento de sus impuestos directos pero solo sobre el cinco por ciento de los indirectos tienen autonomía y capacidad de decisión

y esto señorías se mire por donde se mire es un muro es una barrera para el desarrollo de un sistema tributario que sea una base de un estado de bienestar avanzado y por lo tanto y teniendo en cuenta que ya en el año dos mil doce

en contra del aumento del iva decretado por el gobierno de madrid

inste al gobierno a que reclame todas las competencias competencias plenas

lehendakari lo que viene a decir y a plantear eh bildu con su iniciativa es básicamente lo siguiente como consecuencia de la insuficiencia de recursos como consecuencia de la bajada de la recaudación en euskadi o mejor dicho y más concretamente como consecuencia del incremento de la recaudación por debajo de lo esperado durante el dos mil quince lo que debe hacerse

las diputaciones forales y el conjunto de las instituciones vascas es incrementar los impuestos y a nosotros esto nos parece digamos una propuesta simple y simplista además de

si efectivamente leemos qué es exactamente lo que se propone es evidente que eh bildu nos propone no solamente una propuesta simple y simplista sino también inconcreta nos dice o nos viene a decir que todos los problemas se resuelven incrementando impuestos sin embargo obvia presupuestarias o económicas que pueden tomar las diferentes instituciones vascas para no solamente mantener el estado de bienestar sino

y en este momento crear empleo digno estable y de calidad y hacer posible que euskadi crezca que se cree riqueza en definitiva para que también las empresas generen más beneficios y como consecuencia de ello más impuestos lo cierto es que a finales del año dos mil trece todo el mundo lo sabe el partido nacionalista

relación a lo que tenía que hacerse en relación a los impuestos y llegaron a un acuerdo en materia de fiscalidad un acuerdo al que se sumó también el partido popular nosotros llevamos

llevábamos varios años pidiendo una reforma fiscal y hemos peleado durante largos años también para que se pudieran poner en marcha una serie de medidas

y el partido socialista de euskadi a la que después se sumó el partido popular contenía elementos que a nosotros nos parecían interesantes y como consecuencia de eso en aquel debate monográfico sobre fiscalidad de finales del año dos mil trece apoyamos bastantes de esas propuestas que se planteaban en ese acuerdo también dijimos que eran propuestas que iban en la buena dirección pero que eran insuficientes y a día de hoy venimos a plantear básicamente lo mismo a día de hoy hay margen más que suficiente como para implementar medidas fiscales que hagan posible que efectivamente euskadi tenga una política fiscal

y justa y también hay margen de maniobra para que se puedan implementar

más contundentes de lucha contra el fraude fiscal por lo tanto a pesar de que efectivamente se llegó a una reforma fiscal muy recientemente lo cierto es que todavía

como en lo que se refiere a la lucha contra el fraude fiscal algunas de estas medidas pendientes las hemos defendido de hecho incluso después de ese acuerdo entre el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y el partido popular sin embargo cierto es que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi tienen este asunto cerrado creo que el hecho de que no hayan presentado ninguna enmienda también viene a demostrarlo y el partido popular únicamente quiere abrirlo pero para ir en la dirección contraria es decir para bajar impuestos y efectivamente el gobierno

como perfectamente quedó claro en aquella interpelación tiene este asunto cerrado no está en la agenda hablar absolutamente de ello además también hemos defendido la idea de que sea este parlamento quien sea quien decida la fiscalidad

durante años y que seguiremos defendiendo en el futuro bien a través de la indispensable reforma constitucional

a través de la reforma de la ley de concierto económico pero nos hemos querido centrar

en lo que pensamos que puede hacerse ya y ya digo que lo planteado por eh bildu es una propuesta simple simplista que se queda

y que además es inconcreta porque viene únicamente a decir que hay que incrementar impuestos pero

y además viene a señalar algo que nosotros consideramos que es absolutamente falso viene a señalar que una reforma fiscal produciría

y se resolverían con ella todos los problemas y sin embargo se deja en el tintero asuntos de extraordinaria relevancia por eso nuestra enmienda que hemos nosotros querido reflejar en nuestra enmienda

las distintas instituciones vascas diputaciones forales y gobierno vasco para no solo mantener el estado del bienestar en ese sentido digamos que es poco ambiciosa la propuesta de eh bildu habla de mantener el estado del bienestar nosotros pensamos que no

hay que fortalecerlo habida cuenta los recortes que se han producido en los últimos ejercicios y ante la amenaza de que se produzcan nuevos recortes en el corto plazo ayer mismo se celebró la reunión del consejo vasco de finanzas donde efectivamente se confirma que la recaudación

es posible que se puedan producir recortes o al menos existe esa amenaza y lo que venimos a decir nosotros es que se pueden hacer cosas para que no haya recortes ni el corto ni el medio plazo y no solamente para que no haya recortes o el medio plazo sino que incluso para que se fortalezca el estado del bienestar y eso es lo que hemos querido recoger en nuestra enmienda una nueva reforma fiscal o nuevas medidas para luchar con el fraude son medidas necesarias pero son medidas claramente insuficientes de ahí que yo hablase del análisis simplista que realiza eh bildu y de la propuesta simple e inconcreta que plantea se pueden hacer más cosas y de ahí nuestra enmienda nosotros lo que proponemos es instar

a facilitar el crecimiento económico y la creación de riqueza y de empleo digno y de calidad a fortalecer el estado del bienestar a defender

y la brecha social a través evidentemente

políticas fiscales y presupuestarias que sean necesarias y creo que estaría muy bien que hoy un día después de la reunión del consejo vasco de finanzas teniendo en cuenta los datos de los que disponemos este parlamento

a esto que nosotros planteamos en nuestra enmienda el objetivo que a veces olvidamos tiene que ser crear riqueza el objetivo facilitar el crecimiento económico no solo basta con redistribuir la riqueza de la que disponemos sino que se trata también de crear riqueza de ayudar a nuestras empresas poner los mimbres para que puedan fortalecerse y mejorar sus resultados

más impuestos se trata de recaudar más se trata de crear empleo estable digno y de calidad se trata de priorizar las inversiones productivas

y ciertamente dedicar más a la salud más a la educación más al gasto social hacer posible la justicia social

y a la brecha social y a la pobreza que sufren miles de ciudadanos vascos pero todos estos problemas no se resuelve únicamente con una reforma fiscal

de los impuestos hay otras alternativas por lo tanto a la subida de impuestos genérica e inconcreta por otra parte que plantea eh bildu

no implica que quien tenga esas competencias fiscales vaya a elaborar una buena política fiscal en parte de su intervención ha venido a plantear por lo tanto nosotros lo que planteamos es todo esto que está recogido en esta enmienda pensamos que se pueden reducir los gastos superfluos pensamos que se debe reformar el entramado institucional que nos cuesta según un estudio del gobierno anterior sus duplicidades

pensamos que se puede reformar y modernizar el sector público societario pensamos que sigue habiendo mucho gasto innecesario que sigue existiendo pensamos que hay partidas que pueden revisarse destinamos más de cien millónes de euros a la e i te be destinamos más de cien

a la política lingüística en fin llevamos a cabo todavía a día de hoy obras que no son necesarias etcétera todo esto es lo que tiene que cambiarse todo esto es lo que creemos que debe hacerse en los próximos meses

es posible que sea necesaria una nueva reforma fiscal pero desde luego se pueden hacer muchas otras cosas que son las que hemos intentado recoger nosotros en nuestra enmienda

presupuestarias políticas y económicas para facilitar el crecimiento de euskadi no solamente se trata de redistribuir la riqueza sino de crear riqueza esa es la vía pensamos nosotros necesaria para euskadi y ahí evidentemente tanto este gobierno como las diputaciones forales

muchas gracias señora presidenta bueno no creo que nadie se sorprenda si anunciamos nuestro voto en contra de la iniciativa que se ha

solo decir que nosotros no nos sumamos a la reforma pnv psoe nosotros modificamos aquella reforma para rebajar la subida de impuestos que se preveía para rentas más bajas lo digo por comentar y que quede claro porque las generalidades como tales pueden dar lugar a equívocos yo creo que

una reforma fiscal fundada en la justicia social con más progresividad a estas alturas del siglo veintiuno del dos mil quince está previsto incluso en la constitución del setenta y ocho verdad es evidente que tenemos un sistema fiscal en el que paga más el que más gana paga menos el que menos gana e incluso los que ganan poco

no pagan nada y el problema que se está planteando que es real es el problema de falta de ingresos de las administraciones de todas las administraciones

el desempleo el paro el cierre de empresas y que las empresas no ganan dinero

pero esto lo sabemos todos hace mucho tiempo y lo que nos propone hoy eh bildu es que hay que subir los impuestos y nos cita como presión equivalente global creo que el paradigma de todos me ha puesto usted noruega

presiona y el que más se recaudaba yo recuerdo que noruega un zurito hace unos cinco años costaba ocho euros

cuando estamos hablando aquí de los impuestos indirectos y lo que se grava y lo que no se grava y la presión fiscal hay que hablar de qué impuestos

aumentando esa presión fiscal y en este caso hasta donde yo recuerdo eran los indirectos

eran esos los impuestos que incrementan esa presión fiscal y cuando se nos dice además o se propone o yo

pues uno ya no termina de entender nada porque es que es el único impuesto que hoy está dando mayores ingresos porque no hombre

cuando a pesar de que según el consejo vasco de finanzas las previsiones de ingreso

son menores de las previstas pero así y todo se va a recaudar un cuatro por ciento más y el año que viene se prevé recaudar un cinco por ciento más un cinco y pico

un diez por ciento más un diez por ciento más y eso es a costa de los bolsillos de los ciudadanos es decir las administraciones vascas en dos años van a tener un diez por ciento más de ingresos los ciudadanos van a tener en el bolsillo

porque esto funciona así es decir el dinero de los impuestos sale del bolsillo de los ciudadanos evidentemente de los que más ganan porque ese es el sistema que tenemos

ni empleo y eso está demostrado en muchos sitios es más subiendo impuestos a veces se recauda menos yo me acuerdo lo que ocurrió aquí con las sicav en el país vasco y no fue una idea de bildu fue una idea del partido nacionalista vasco de subir las sicav que se recaudaba poco y al año siguiente recaudamos cero

eso sí tenemos un impuesto que las grava mucho mucho más que en el resto recaudación

ni siquiera como se recauda más se recauda más creando empleo

que vayan dirigidas a la creación de empleo estable de futuro y por eso nosotros en aquella reforma varias de las modificaciones que hicimos eran del impuesto sobre sociedades

ayudar a las empresas a crear empleo estable otra cosa es que lo hagan o no lo hagan y está claro a la vista de la recaudación que si pese a que la economía sube

pues es evidente que los ciudadanos no se están viendo beneficiados

y por eso nosotros planteamos oiga ya que se está recaudando más vamos a devolverles a los ciudadanos parte de eso es más por qué no hacemos como se está haciendo en otros sitios que es

porque si se está recaudando más y los ciudadanos no ganan más

al servicio de los ciudadanos y por eso le digo y le repito

precisamente es la contraria o sea nosotros entendemos que para crear riqueza para recaudar más

puedan disponer de más dinero que son los que al final crean los impuestos

y cuanta más gente trabajando haya con empleos dignos y estables más se recaudará como ha ocurrido otras veces y nosotros en esta comunidad autónoma hoy nos estamos quedando cortos y vamos ya a remolque en españa en el

pero en cuanto se puede se baja para qué para favorecer esa creación de empleo y ese movimiento de la economía que al final es lo que va a dar más ingresos y lo que está dando más ingresos

tenemos el problema de que dónde estamos fallando pues en la creación de empleo incluso tenemos un consejero que nos plantea que bueno con las jubilaciones y tal iremos acabando con el desempleo pues bueno es un sistema

que queremos para este país nosotros con eso no estamos de acuerdo nosotros lo que pensamos es que hay que fomentar la creación

de riqueza porque sin riqueza no hay riqueza que repartir eso es evidente verdad pero lo que hay que hacer es fomentar la creación de empleo

y eso lo sabemos todos hasta ustedes lo saben hasta ustedes lo saben y no me hable

y otra cosa es que en gipuzkoa precisamente grava la creación de empleo lo cual

a esa creación de empleo que supongo que todos buscamos porque cuando hablamos del estado de bienestar social supongo que estamos hablando de que todos queremos

y tengamos paro cero digo yo que esa es la finalidad de todos desde luego es la nuestra y por eso vamos a votar en contra de su iniciativa eskerrik asko damborenea jauna

esta moción es el tiempo en el que la ha presentado el tiempo más bien en el que se va a discutir mucho más que el contenido

que los caminos se cruzan y que cuando uno tiene una intención pues en la escena aparecen otras y esto es lo que ha ocurrido en las últimas cuarenta y ocho horas en la política vasca cuando usted presentó esta iniciativa se supone que pretendía hacer una fiscalidad diferente mayor

acompañándola a la que puede ser la media europea queriendo subir esa presión fiscal en cinco puntos en el plazo de dos años curiosamente en este tiempo desde que usted hace esta iniciativa el gobierno vasco nos anuncia varias cosas primero su portavoz hace

los recursos que estaban previstos para los gastos presupuestarios nos dice además que va a ver ajustes y recortes y ayer se celebra el consejo vasco de finanzas en un clima en el que

de comprobar de saber si efectivamente esas declaraciones del portavoz del gobierno vasco estaban sustentadas

las tres diputaciones efectivamente en cierto modo esto

y luego explicaré porque en cierto modo ya que ayer el consejo vasco de finanzas lo que viene a decir es que en el año dos mil quince y según las previsiones de recaudación álava más o menos cumplirá con las previsiones previstas

en la senda del crecimiento que mediante la reforma fiscal se aplicó a los ingresos de los presupuestos y que sin embargo tiene un agujero de doscientos trece millónes de euros bueno ayer también sale el consejero

diciendo primero algo muy curioso que me gustaría que lo explicara el gobierno con más detalle

no deja de ser una propina algo así como calderilla no tiene mayor importancia además le rectifica al portavoz del gobierno al señor erkoreka y dice

y además lanza otra perla que también el gobierno tendrá que explicarla y es que parece que ahora se ha convertido en un mérito la inejecución presupuestaria es decir que viene a plantear

de que el presupuesto que ha aprobado este parlamento sea un presupuesto que no se ejecute en su totalidad y por lo tanto no es necesario

es un planteamiento político de un despropósito extraordinario y por eso decía que

para discutir sobre la fiscalidad aunque en sentido diferente al que nos planteaba la portavoz

bien estando así las cosas yo quiero recordar que con el impulso socialista con el tesón socialista con la machaconería socialista

especialmente del partido nacionalista vasco en el año dos mil trece se produjo una reforma fiscal una reforma fiscal que facultaba para cuatro cosas para el sostenimiento y la garantía de los servicios públicos para la corresponsabilidad fiscal y

para la aportación según renta y para evitar la ilusión fiscal y aportar más con las rentas más altas es decir la reforma fiscal del año dos mil trece tiene cuatro objetivos que son perfectamente válidos para poder hacer una política de atención

en el país vasco porque da todos los instrumentos

se aprobaron treinta y dos resoluciones y que dentro de esas treinta y dos resoluciones todavía hay aspectos que se podrían mejorar y otros diría que casi casi que poner en funcionamiento porque

que aquellas resistencias políticas para que se produjera aquel pleno de política para hacer aquella reforma fiscal después

a las propias diputaciones forales que son las que tienen que ejecutar la política presupuestaria o sea la política fiscal aunque también es cierto que el gobierno tiene algunas competencias

fueron aprobadas con distintos consensos en esta cámara hablamos de la armonización fiscal y hay una resolución al respecto de la colaboración interinstitucional y hay una resolución al respecto de la fijación de objetivos evaluables

hemos insistido en ella y se ha resistido todo el mundo a que esto

de gipuzkoa se negó a establecer un criterio de recaudación fiscal cuando en otras agencias tributarias se hace y desde hace muchísimos años entre otros en la agencia tributaria de españa planteamos también mediante aquellas resoluciones que se actuara

patrimoniales en nuevas tasas es decir era una reforma fiscal muy completa que además

para diseñarla bien para ponerla en funcionamiento para hacer todas las previsiones que sobre ella se quisiera y el dos mil quince obviamente era el año en el que había que ofrecer los resultados bien

el gobierno este gobierno planteó que en el año dos mil quince se iba a crecer en un dos coma cinco por ciento que iba haber

e incluso estas previsiones a mediados de este año dos mil quince se revisaron al alza y una posición que manifestó el consejero de hacienda pública

más incluso muy recientemente por eso lo curioso de estas últimas cuarenta y ocho horas muy recientemente volvió a insistir

claro aquí surge una pregunta importante

usted no va a tener todos los recursos que había previsto y sin embargo esto no afecta para nada a los objetivos económicos y de empleo que tiene el gobierno con lo cual

inútil no va a ser necesario para cumplir objetivos económicos y para cumplir objetivos de empleo yo le podría decir con doscientos trece millónes de euros

con doscientos trece millónes de euros en circulación gastándolos en políticas de empleo por tanto estamos ante una situación en la que yo creo que

alguna explicación como responsable de un gobierno que un día el portavoz dice una cosa otro día el de hacienda dice otra cosa pero en medio lo que aparece es un agujero

y que parece que ayer pasó sin pena ni gloria por el consejo vasco de

finanzas efectivamente bien entonces

situación hay dos haciendas que cumplen hay una hacienda

que pincha hay una hacienda que no

no sabemos cómo afecta eso al impuesto de la renta cómo afecta al impuesto de sociedades cómo afecta a los impuestos más importantes y por eso nosotros queremos recordar algunas cosas más y fundamentalmente cuáles son nuestros objetivos los objetivos del partido socialista desde que se inició esta legislatura fueron fundamentalmente tres el primero parar a este gobierno que quería hacer unos recortes brutales

en las políticas sociales en las políticas de empleo el segundo

de la crisis económica necesitábamos una política fiscal diferente y por lo tanto ese era nuestro segundo objetivo y nuestro tercer objetivo fue hacer un compromiso político en el que nosotros hemos cumplido un objetivo político en el que se basaba en que hubiera presupuestos

presupuestos en el año dos mil quince un acuerdo político de políticas de empleo y de garantía de los servicios públicos y de las políticas sociales y esto es lo que precisamente en estos momentos está en riesgo por lo tanto el lehendakari debe de dar respuesta debe de dar la cara

que una diputación diga una cosa otra otra otra otra que al final son diputaciones que también gobernadas por el partido nacionalista vasco

que otro consejero diga otra y aquí la clave es oiga dónde están esos doscientos trece millónes dónde están esos doscientos trece millónes por qué

ha pinchado si es verdad que ha pinchado o no o si es una estrategia para que

sea más elevada sea diferente y entremos en una senda

para el año dos mil dieciséis en este parlamento incluso en las propias diputaciones forales en las que se pueda ir a la baja o intentar que se vaya a la baja bien nosotros no vamos a participar ni vamos a admitir ningún recorte en política educativa sanitaria social

investigación etcétera esta ha sido la política que ha definido

con el partido nacionalista vasco y con el gobierno vasco para que ciudadanos y ciudadanas del país vasco tuvieran mejores políticas en el año
dos mil quince amaitu mesedez termino ahora mismo y por lo tanto de esto

está emplazado a dar una explicación de qué está pasando en las diputaciones qué está pasando en el gobierno porque esta situación no es de recibo

gizarte politikak bermatzea dela el modelo vasco actual no es

que propicie la brecha social según lo indica el índice gini en segundo lugar en la unión europea después de suecia y no haciendo lo que ustedes hacen aportar unos datos de forma sesgada que lo que nos llevan a pensar es que el modelo que bildu está promoviendo ante el desconocimiento total de cuál es su modelo social es el que se basa en el copago de alemania

o el sistema de pensiones de noruega usted

en su integridad justizia

pero consideramos que los datos de los que ahora disponemos deben ser objeto de un análisis que requiere su tiempo no debemos precipitarnos a la hora de tomar decisiones y proponer modificaciones sin haberlas

profundamente las decisiones que en su caso puedan adoptarse deben basarse en rigurosos y exhaustivos análisis de la información disponible

la actuación de las administraciones públicas como hemos dicho debe basarse en la responsabilidad

huir de discursos demagógicos tanto cuando se propone como cuando se propone bajar impuestos con intereses electorales indarrean dagoen zerga sisteman egokitzapenak egitea beharrezkoa bada

cumple en un noventa y siete por ciento con sus previsiones de recaudación

la recaudación del año anterior en un dos coma ocho por ciento

va a ser la recaudación de bizkaia cumpliendo en un noventa y siete por ciento las previsiones de recaudación

a la inejecuciónpresupuestaria todos ustedes saben todas aquellas personas que hayan estado en distintos ámbitos de la administración

ordinaria hace que el presupuesto

no se ejecute en el cien por ciento y eso no lleva detrás una voluntad

no hay una intención de inejecutar de no ejecutar el presupuesto sino que la dinámica presupuestaria ordinaria hace que la ejecución presupuestaria

y en los distintos ayuntamientos mancomunidades diputaciones y gobiernos no sea del cien por ciento no que haya una voluntad o una intención de no
ejecutar amaitzen

el gobierno dice tendrá que decir qué va a hacer con ese dinero que no está

en años en los que la situación no era la de ahora la inejecución presupuestaria fue superior al tres por ciento por esa dinámica presupuestaria ordinaria no por la necesidad de ajustar el presupuesto y desde luego es mucho más de lo que en este caso se va a necesitar eskerrik asko

un día más señor maneiro si usted lo que no quiere es encontrarse conmigo en el camino

más imaginativas porque fíjese señor maneiro su propuesta es

a fortalecer el estado del bienestar a defender la justicia social a hacer frente a las desigualdades y a la brecha social a través de las medidas políticas fiscales y presupuestarias

porque si esto es concreción usted mismo

nada que no podríamos haber suscrito cualquiera en genérico nosotros íbamos a cuestiones mucho más concretas que lo dejábamos abierto claro

porque somos conscientes de que estas cuestiones hay que tratarlas y poníamos un camino y usted vuelve a decir que nosotros creemos que todos los problemas se van a solucionar incrementando los impuestos yo no he dicho eso ni una sola vez ni una

tributarias cierto pero otros compañeros míos y compañeras mías hablan en otros momentos de otras políticas públicas que tiene que hacer este gobierno para mejorar el estado del bienestar en otras cuestiones sanitarias de políticas de empleo

incluso de enriquecimiento del tejido industrial

de políticas tributarias que no he dicho que son la panacea ni que es la solución ni que son los polvos mágicos no señor maneiro he dicho que es la base de un buen estado del bienestar y a partir de ahí construyamos produzcamos riqueza y tengamos un estado del bienestar moderno y

pero yo no he dicho lo que usted ha mencionado que hay margen para implementar medidas fiscales pues claro eso es lo que estoy diciendo pero vayamos a ello vayamos a ello

no vamos señor damborenea usted sabe muy bien que usted y yo que lo llevamos con filosofía pero usted y yo no vamos a estar de acuerdo nunca

eso es de sobra conocido para ustedes la solución es bajar los impuestos porque según ustedes hay más dinero en los bolsillos de los ciudadanos luego que haya colas en los hospitales

con los treinta o cuarenta euritos más que se tienen en la cartera

no se va a solucionar la carencia de un buen estado del bienestar

a todos los políticos es que ha dicho tantas cosas que usted sabe que nunca vamos a poder llegar a un entendimiento

que ya tenemos un sistema fiscal en el que más paga el que más tiene nuestra propuesta dice

en aquellas cuestiones en las que no se ha profundizado en la riqueza en el capital improductivo usted sabe también como yo que las empresas no pagan

en proporción si usted los pone en una balanza no lo hacen y que

tienen múltiples caminos para buscar para no pagar los impuestos

ni hablemos de las salidas y puertas laterales que tiene el impuesto de sociedades que está en vigor en los tres territorios de esta comunidad autónoma por lo tanto

pero solo para dirimir sus cuestiones con el partido nacionalista vasco sus cuestiones de lo que acordaron

y lo que siempre vienen hacer es dirimir los acuerdos que tiene con el partido nacionalista vasco

ni palabra y el pnv pues poco más siempre lo mismo

que estamos con unos de recaudación similares a los del dos mil ocho con una disposición presupuestaria mucho menor

que más del treinta por ciento de la población que está en riesgo de pobreza está fuera del sistema de ingresos eso es una realidad y está ahí la pobreza real en euskadi es del cinco coma nueve cuando en el dos mil ocho era del cuatro coma dos que el índice de gini nos coloca donde nos coloca sí pero usted sabe

que no es el correcto está en sentido inverso a un buen sostenimiento del estado del bienestar porque el índice del gini tampoco señora gorospe hay que tomarlo aislado y en relación a cuáles son las prioridades de este gobierno es que no soy yo la que lo ha hecho es este gobierno el que lo hizo y fue el lehendakari en el que en su intervención

fue el déficit y en tercera posición el bienestar de la ciudadanía y señora gorospe yo también sé lo que hay que hacer cuando uno gestiona

pero esa nunca puede ser la prioridad de unos presupuestos es una herramienta señora gorospe una herramienta la prioridad es el bienestar de la sociedad y para ello uno se tiene que preocupar de tener unos presupuestos saneados y para tener unos presupuestos saneados hay que preocuparse

de verdad un sistema tributario que sirva de verdad como sostenimiento de un estado del bienestar real
y no de un estado del bienestar de circunstancias un eskerrik asko estado del bienestar de cumplir el expediente

sí gracias presidenta señora pinedo no ha convencido usted a nadie ni a los que quieren subir impuestos

y yo he insistido en que efectivamente su propuesta tal como estaba planteada era muy simplista y no iba a la raíz de los problemas usted lo que ha venido a plantear básicamente puesto que tenemos insuficiencia de recursos y hay que mantener el estado del bienestar lo que tiene que hacerse es impulsar una reforma fiscal fundada en la justicia social eso suena bastante

una reforma fiscal para asegurar la justicia social y que paguen más los que más tienen etcétera etcétera etcétera esto

inconcreta e incompleta lo que yo creo que falla

porque ya digo usted lo que viene a plantear es puesto que tenemos recursos insuficiente lo que hay que hacer es subir los impuestos a quién hay que subir los impuestos cuánto hay que subir los impuestos a quienes exactamente hay que subir los impuestos qué impuestos hay que subir etcétera he venido a rebatir con mi enmienda hombre las enmiendas de los grupos suelen ser habitualmente más genéricas que la iniciativa original aunque en este caso ni siquiera eso es decir quien presenta una iniciativa concreta tiene que intentar que sea lo más completa posible lo más coherente y lo más exacta y creo que es en lo que claramente usted ha fallado

ha convencido a nadie creo que el señor prieto ha dicho una cosa interesante y una inexactitud

por un lado es interesante lo señalado por el señor prieto en relación efectivamente a la inejecución presupuestaria

muy interesante ayer supimos que efectivamente este gobierno va a disponer si no me equivoco de ciento cuarenta y cinco millónes de euros menos para el año dos mil quince y efectivamente tiene que ser el gobierno vasco y

quien explique en esta cámara qué es lo que va a hacer dónde va a recortar

se van a ver afectadas con esa disminución de los ingresos y evidentemente nosotros vamos a plantear interpelación al consejero de economía al consejero de hacienda o al propio lehendakari para que nos explique esto lo que no puede ser es que se produzca una inejecución presupuestaria y usted señora gorospe venga a decirnos aquí que esto es habitual o que en gobiernos anteriores sucedió lo mismo más allá de que se haya

una ejecución presupuestaria porque los presupuestos por cierto se hicieron mal en lo que se refiere a los ingresos lo que tiene que hacer el gobierno es explicar qué va a pasar

ciento cuarenta y cinco millónes de euros y esto es lo que tiene que explicar evidentemente en el próximo pleno de control el lehendakari o el consejero gatzagaetxebarria son ciento cuarenta y cinco millónes de euros dónde se va a recortar qué se va a dejar de ejecutar qué se va a dejar de hacer se va a recortar en educación

se van a suprimir las partidas clientelares que pactaron ustedes con el grupo socialista y que beneficiaban a determinados ayuntamientos del partido socialista va a afectar a determinadas inversiones productivas evidentemente esto es lo que merece

esto es un asunto muy serio por un lado que se elaboren mal los presupuestos que no se acierte en lo que se refiere a la recaudación más allá de que se haya incrementado se ha incrementado

y evidentemente el asunto de la inejecución presupuestaria el hecho de que esta se produzca y la falta de

en el próximo pleno de control por otro lado y en relación también al señor prieto decía que gracias a la machaconería socialista

la resistencia de todos se pudo poner en marcha una reforma fiscal y señor prieto sabe usted que esto es inexacto esto no es así nosotros defendimos ya desde el año dos mil nueve año dos mil diez una reforma fiscal preguntamos al lehendakari lópez preguntamos e hicimos interpelaciones planteamos propuestas concretas defendimos medidas para luchar contra el fraude fiscal

en innumerables ocasiones la puesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y el señor lehendakari vino a decir continuamente y permanentemente que no que esa reforma fiscal no era necesaria por lo tanto machaconería venciendo las resistencias de todos el caso de upyd que ya digo durante largos años en fin se encontró en esta cámara en absoluta soledad

la enmienda de upyd es perfectamente asumible por todos los grupos y puesto que se va a rechazar la iniciativa de eh bildu pido a los grupos

de nuestra enmienda decía la señora gorospe que se trata de analizar los datos de los que disponemos reflexionar y tomar decisiones creo que es incuestionable que las diferentes instituciones vascas y en concreto el gobierno vasco evidentemente tiene que hacer cosas como facilitar el crecimiento económico

debe defender la justicia social y tomar todas las medidas políticas económicas presupuestarias y fiscales que sean necesarias para garantizar

razonable estaría muy bien que los grupos de esta cámara le instaran al gobierno

muchas gracias señora presidenta también a veces sería conveniente que nos pusiéramos de acuerdo en lo que significan algunos términos

si se entiende por armonización fiscal la uniformidad fiscal y que todos tengan que tener exactamente el mismo impuesto

por armonización fiscal hay que entender que hay que tener exactamente los mismos impuestos que con quien estás armonizado da qué pensar

tiene aquí en cualquier caso el partido nacionalista vasco nos habla de la inejecución

de porqué a treinta y uno de agosto la disposición del gasto en inversiones en los hospitales previstos era cero

y el señor consejero nos dijo desde esta tribuna que a ver qué datos manejábamos pues los que nos manda el gobierno los que nos mandó el gobierno

estamos hablando de cancelación de partidas o estamos hablando de aplazamientos al ejercicio siguiente

no es lo mismo cancelar partidas por ciento cuarenta millónes de euros porque no se ejecutan o no se van a ejecutar o se decide no ejecutar que aplazar

para el ejercicio siguiente que es evidente que será con cargo a ingresos del año siguiente por eso no es lo mismo y por eso cuando se habla aquí de que con la inejecución pues ya lo arreglamos todos pues habrá que ver en qué consiste esa inejecución y yo lo que no entiendo hay algunas frases de bildu que qué tendrá que ver que los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo con que haya que cerrar hospitales qué tendrá que ver

me dice usted las empresas pagan menos que los ciudadanos como si las empresas fueran algo etéreo

detrás de las empresas hay ciudadanos que son los accionistas las empresas cuando tienen un beneficio pagan el impuesto de sociedades lo que queda

físicas que no sé usted si son físicas los accionistas al final siempre hay una persona física que lo que se llama el dividendo que lo cobra y ese lo llega al irpf por lo tanto los ingresos que generan las empresas oiga de entrada de entrada están sujetos a esos dos al irpf siempre

y en medio al impuesto de sociedades es así

en ese caso los accionistas claro si nos centramos un poco en cómo funciona esto

es muy posible que nunca nos pongamos de acuerdo en el método supongo que en el fin sí

yo si hay alguien que pueda estar en desacuerdo con lo que ha propuesto el señor maneiro supongo que nadie en esta cámara

y ahí es donde estamos en desacuerdo porque lo que ustedes proponen es precisamente lo contrario que no se llegue nunca a eso que no se llegue nunca a eso

fiscal y social es el empleo es el empleo y nosotros entendemos que la política fiscal que además de recaudar

a las administraciones tiene que ir dirigida a la creación de empleo y de riqueza como política fiscal y social y por lo tanto no creo que vamos no voy a anunciar nada nuevo sino que como no sé cuál es el método que propugna el señor maneiro
para llegar a esa finalidad pues nos abstendremos a su moción eskerrik asko damborenea jauna

sí presidenta varias cosas al señor maneiro la primera solamente por

en las actas de las sesiones

se planteaba la reforma fiscal una reforma que nunca encontró apoyos suficientes para poder traerla y que fueron unas circunstancias cambiantes las que después en la legislatura presente hicieron posible que esto se abordara por lo tanto en fin debe corregir un poco

si es solo un problema de memoria porque si no hay maldad en la afirmación porque efectivamente nosotros abordábamos este asunto

finalmente vio la luz en el año dos mil trece aunque

fue una reforma fiscal participada por todos los grupos de la cámara bien una cosa es lo que el gobierno vasco prevé no ingresar en este año que está en torno a ciento cuarenta y cinco millónes según se ha hablado y otra cosa es lo que

y la diputación foral de bizkaia sobrepasa los doscientos millónes de menos recaudación por lo tanto como estamos todavía ante unas cifras que no sabemos si se cumplirán

luego el señor damborenea también ha apuntado alguna idea en relación a esa misma alerta no es lo mismo no recaudar que recaudar más tarde

se hace no es la primera vez que se plantea y en concreto en bizkaia que se da

a ciertas empresas la orientación de que aplacen pagos para que la recaudación se haga de otra manera y los presupuestos también en fin estas cosas están sobre la mesa porque han estado sobre la mesa y vuelven a estar sobre la mesa y por eso

nos explicara qué está pasando en el gobierno qué está pasando en las diputaciones qué está pasando con la recaudación ya que lo que nos dicen sus consejeros es contradictorio solamente en el plazo de veinticuatro horas en relación con la señora

simplemente decirle que la reforma fiscal que se empezó en el año dos mil trece todavía tiene mucho margen tiene margen

por ejemplo en la lucha contra el fraude fiscal hemos querido hacer una evaluación y plantear objetivos de recaudación y no ha sido posible entre otras cosas porque bildu se negó

el partido nacionalista vasco ninguna de las tres diputaciones cuando esto lo planteamos el año pasado quería entrar en ese asunto imposible el hacer esas previsiones de recaudación cuando la realidad con la agencia tributaria española desde el año dos mil siete demuestra que

son evaluables y que luego además se da cuenta se rinde cuentas sobre esos objetivos y luego además la reforma fiscal tiene mucho campo de acción por lo tanto si con la reforma fiscal del dos mil trece en este momento

claro plantearse una reforma fiscal al alza cinco puntos más cuando la recaudación con la actual no está funcionando

es encargarle que la haga el gobierno que es lo que pone en el punto primero

una reforma fiscal progresista al gobierno

ese tipo de reforma fiscal en todo caso lo podrán hacer las formaciones políticas progresistas aquellas que ponen más el acento en los servicios públicos en las políticas sociales en las economías salariales que aquellas otras que ponen en las rentas del capital por ejemplo

y que me la proponga el gobierno vasco y las diputaciones oiga yo eso no lo encargo al gobierno vasco y a las diputaciones ni harto de coca cola es decir

como hemos planteado los socialistas durante muchos años y finalmente la planteamos en el dos mil trece fue proponiendo figuras tributarias proponiendo diferentes tipos proponiendo una determinada forma de luchar contra el fraude fiscal

esto cada uno tiene que hacer sus deberes y no encargarlos a los demás y por último señora gorospe

nosotros somos responsables de una política de estabilidad institucional en este país desde una posición en el caso del país vasco de oposición para que la ciudadanía que es nuestro objetivo y es a quien servimos tengan políticas publicas políticas sociales etcétera

que además no se va a ejecutar el presupuesto luego lo puede

pero yo tengo la necesidad de saber cómo va a afectar eso a la sanidad si va a afectar

a la investigación si va a afectar al empleo si va a afectar porque yo tengo un compromiso político y un compromiso político que lo tengo contraído con ustedes y que yo lo cumplo

y yo lo estoy cumpliendo pero ustedes me están anunciando con que no lo van a cumplir y precisamente por eso la preocupación profunda de nuestro partido
que entre otras cosas ha provocado que nuestra secretaría general haya pedido al lehendakari amaitzen joan prieto jauna una entrevista

esto no puede pasar por los medio de comunión como si fuese una anécdota más o un detalle más

sino como algo muy importante que afecta a la política que se hace en este parlamento a la que hace su gobierno a la que afecta a nuestro compromiso

es una estrategia de desarrollo humano e integrador que sitúa el compromiso con las personas

de la acción del gobierno y añadió que la salud la educación y las políticas sociales son los puntales de nuestro modelo humano argi eta garbi

a la inejecución y vuelvo a darles los datos que les he dado antes los dos planteamientos uno la inejecución es algo habitual en la dinámica presupuestaria ordinaria de todas las administraciones públicas no hay administraciones que ejecuten el cien por ciento

del dos mil siete dos mil ocho que rondaba el tres por ciento

no pensaran que era con voluntad de hacer ajustes en absoluto sino que es la dinámica ordinaria son múltiples partidas

y ustedes saben perfectamente otra cosa es que la dialéctica política y la confrontación política les lleve otro enfoque otro planteamiento pero ustedes saben perfectamente que esto es algo habitual en muchas administraciones públicas y también saben ustedes que el impacto en el presupuesto en un presupuesto de diez mil seiscientos millónes como es el presupuesto del gobierno vasco

son perfectamente asumibles el señor prieto decía que no hay consistencia en la información que se está ofreciendo en la medida en la que décimos

que hay un crecimiento de la generación que se espera hoy previsiones de generación de empleo y sin embargo la recaudación no tiene el mismo comportamiento pero usted también sabe perfectamente

puede deberse a distintas razones no es lo mismo que proceda de la exportación que sí que puede generar empleo pero que no tiene la misma incidencia en la recaudación que puede tener por ejemplo

procede del consumo interno hablaba usted del compromiso que tenemos no dude en ningún caso de que el partido nacionalista vasco el gobierno vasco liderado por el lehendakari urkullu cumplirá con los compromisos adquiridos

es el modelo y la vía por la que en este país tenemos que seguir eskerrik asko eskerrik asko gorospe

sobre las medidas necesarias para proteger adecuadamente a los parados de larga duración un asunto más de los muchos que tratamos aquí dos enmiendas

no sé si los no enmendantes estaban de acuerdo con la iniciativa

a favor de la misma o no tienen nada que decir en todo caso serán los últimos

hace dos semanas tratábamos la precariedad laboral otras veces el paro juvenil la pérdida de poder adquisitivo de los salarios

con el concepto de economía como la ciencia que estudia los métodos para utilizar eficazmente y satisfacer las necesidades materiales humanas

a día debate a debate que hay colectivos enteros que no acceden a esos recursos y que no logran efectivamente un reparto equitativo de esa riqueza a nosotros nos gustaría que aquí se adoptaran acuerdos sobre estos temas que fueran unánimes

claro llamamos paro de larga duración y no deja de ser un eufemismo

el paro de larga duración como ha dicho la señora arrondo se está cronificando

a todos los efectos dos de cada tres trabajadores que pierden su empleo no lo van a volver a encontrar y por lo tanto entendemos que

el paro de larga duración porque no va a haber una denominación que hable de paro de infinita duración es por lo tanto como digo un paro estructural y constituye una auténtica

donde el parado de larga duración ya con esa etiqueta con esa campanilla

acceder al mundo del trabajo o al mercado laboral como se dice ahora y qué hacer qué hacer las políticas activas de empleo suele ser una de las respuestas a ello pero las políticas activas de empleo es como un hijo no deseado para este gobierno y para el partido que lo apoya la semana pasada

cómo después de treinta años somos la última comunidad autónoma en recibir esta transferencia a pesar de eso también hay un auténtico

del partido nacionalista vasco al final llega dicha transferencia

muertas están muertas no voy a hablar de ellas porque no es el objeto de este debate en concreto pero podemos hablar de cómo estamos ahora sin orientación con las entidades colaboradoras

pero en definitiva el gobierno aún así no va a hacer nada no va a hacer nada porque reiteradamente le escucho decir como argumento de autoridad que tiene un gran respaldo electoral eso le da un poder institucional y ese argumento de autoridad por sí mismo

en buenas políticas y esto además tienen digamos la arrogancia de espetarlo generalmente a los grupos más minoritarios por lo tanto

impulsar las iniciativas pero

de que prosperen y esto nos lleva debo decirlo a afirmar que no es aventurado suponer que si los socialistas no hubiéramos pasado por el gobierno hoy

activas de empleo y por qué presentamos nosotros nuestra enmienda que hace referencia a un acuerdo parlamentario también incumplido el que hablaba de desarrollar legislativamente a través de un pliego de cláusulas administrativas generales la posibilidad

pero es que ese pliego de cláusulas generales administrativas son las que pueden recoger cláusulas sociales cláusulas sociales

a que estos colectivos desfavorecidos hoy hablamos de los parados de larga duración pero podríamos hablar de otros colectivos puedan tener cabida porque efectivamente las políticas sociales

la contratación pública solo tenía en cuenta el objeto del contrato pero debemos de tener en cuenta que la contratación pública constituye un porcentaje muy importante del producto interior bruto y por lo tanto desde ella cabe la posibilidad de respuesta a estos colectivos y cuando invocamos este acuerdo no es por apego a nuestras tesis ni mucho menos sino porque creemos creemos de verdad que constituye un instrumento primeramente legal porque tenemos competencia en desarrollo legislativo

que permite tener un instrumento que no tiene gravamen presupuestario

dar la posibilidad de que en la contratación pública tengan cabida estos colectivos y aquel acuerdo que hablaba de sometimiento a los convenios colectivos

la negociación colectiva y la vigencia de los convenios tiene mucho que ver con esto que hablamos aunque parezca que no están relacionados porque un ejército de reserva como dirían los clásicos un contingente tan numeroso de parados de larga duración presiona a la baja los salarios por lo tanto

la negociación y los convenios colectivos en la contratación pública nosotros no podíamos aceptar

partido nacionalista vasco porque era pues en fin de muy pocas calorías francamente y la propuesta de transacción todavía mucho menos señora arregi porque

sin que se haya declarado solemnemente si tenemos competencia o no para legislar en la materia lo cual terminará siendo para la imagen de esta institución porque siendo como es un tema delicado un tema importante en el que nosotros ponemos

entendemos que se está jugando un poco con ese asunto el debate nos parece interesante y vamos a participar

pero el resultado del mismo no deja de ser en fin un tanto difuso y por lo tanto

en fin echar los balones ya no fuera del campo sino fuera del estadio por lo tanto sí hemos llegado a un acuerdo

lo vaya a cumplir aunque como corresponde a nuestro grupo grupo de la oposición haremos hincapié en que esos acuerdos se cumplan

en la transacción a la que hemos llegado con euskal herria bildu efectivamente hemos omitido mención alguna a cuantías

presupuestarios con el partido nacionalista vasco y nos parecía que podía suponer una distorsión de lo que son esas negociaciones y esos acuerdos en todo caso sí nos parece que por la naturaleza por la entidad y por la importancia que tiene el problema

un reflejo presupuestario específico concreto para saber exactamente en cuanto se cifra el esfuerzo del gobierno por este colectivo de parados

como digo no tengo mucha confianza en que de salir el acuerdo se vaya a cumplir pero nosotros como digo lo vamos a impulsar porque esto estas medidas y otras que se puedan plantear y proponer no van a arreglar seguramente el problema del paro de larga duración no lo van a resolver del todo

que tenga en cuenta estos colectivos y que haga lo posible porque el trabajo que pueda generar desde las administraciones desde los poderes públicos están obligados a promover las condiciones de igualdad y de reparto de bienes materiales

que tiene que el gobierno actuar y nosotros estaremos detrás para empujar